señora ubera usted ha dicho una cosa que francamente para nuestro planteamiento

anillo al dedo usted ha dicho el pan para hoy pero el hambre para mañana

lo utilizaré luego más tarde porque lo ha dicho casi al final y

vamos a ver ustedes en su moción instan a la negociación a retomar la oferta de una fecha concreta etcétera etcétera todos estamos de acuerdo pero yo creo estamos de acuerdo en la negociación pero yo creo que hay veces que se confunde la obligación que tiene la administración

y se pretende que esa obligación se extiende al punto de acordar la

pero lo que no puede tampoco es con el pretexto

de no quieren hablar conmigo no quieren sentarse conmigo etcétera etcétera etcétera

nosotros lo que le pedimos a la consejería de educación es que tome decisiones que negocie sí pero que asuma su responsabilidad

del sistema vasco de educación no está en la mesa de negociación está en el despacho de la consejera por eso nosotros le pedimos que tome

no podemos seguir oyendo la historia de es que conmigo no se sientan es que no quieren es que tal es que cual y es cierto habrá disparidad

pues no sé habrá que llegar a un acuerdo tampoco nos podemos enfrentar a estas huelgas durante mucho tiempo y si es necesario llegar

pero la decisión y lo que nosotros le pedimos a la consejera es que asuma su responsabilidad luego hay otra cosa en su intervención que también nos impide

nos impide unirnos a su planteamiento que es el siguiente usted ha dicho frases como

al hablar de todos los trabajadores a los que usted se refería como implicados con este pueblo de este pueblo etcétera etcétera

de la escuela pública vasca y está singularizando en ellos el pueblo mire esa es la mitad de la escuela vasca la escuela vasca está formada por la parte publica y por la parte concertada los dos tienen las mismas obligaciones las mismas pero no tienen los mismos derechos y es más la escuela vasca concertada

hemengoa no está en huelga y usted sabe que

pública así es que por favor no hagamos esas diferenciaciones porque para la mitad de la población son duras de oír

y también están implicados con este pueblo y cumplen con las mismas obligaciones las mismas que marca la consejería para la pública lo cumple la concertada cierto que con una penosidad mucho mayor

por lo menos entre un veinticinco y un treinta por ciento inferior bueno sigamos por eso hemos preferido

con los grupos que apoyan al gobierno porque desde luego recogen

de pedir la negociación la recogen y

que ya le digo obligación de negociación no es obligación de acuerdo y luego también porque han tenido en cuenta hemos podido incluir un punto que para nosotros es vital y que nos lo van a oír repetir una y otra y otra vez

en educación estamos actuando lo mejor que podemos todos sin duda pero estamos actuando en un escenario muy muy muy inestable y por qué digo esto

en euskadi y en la administración en el gobierno está íntimamente relacionado con lo que está pasando con la natalidad de este país ese es el departamento de educación miren los problemas que en estos momentos tenemos con las haurreskolak

en otros sitios faltan plazas qué es lo que le pedimos nosotros al departamento de educación que por favor haga un estudio

de los grupos del gobierno hemos quitado el plazo pero para planificar en educación para la pública para la concertada para las haurreskolas para los profesores para las infraestructuras es necesario tener un escenario a diez

un escenario demográfico a diez años vista mire tengo unos pequeños datos del eustat en mil novecientos setenta y cinco nacían

en dos mil dieciséis nacen ocho coma cuatro niños por mil habitantes

pero además me parece muy adecuada porque es el momento a partir de esa fecha cuando

se aceleran las nuevas infraestructuras en euskadi y ya no digo cuando después del

en los que empezamos a tener competencias plenas claro tenemos un escenario entonces de que por cada mil habitantes nacían diecinueve niños es que hoy

nacen ocho coma cuatro y además la tendencia es descendente descendente descendente hablemos de convenios

es decir lo que se firma hoy ya no se vuelve a discutir pero hablemos de convenios hablemos de las condiciones laborales de todos no solo de la escuela pública vasca como hacen ustedes diciendo que

baita ere baita hemengoa da baita herrikoia hablemos de todos pero claro lo que no podemos es avanzar cada cuatro años

petachos intentando hacer cosas si no tenemos una idea del escenario de este país del escenario demográfico por lo menos a diez años vista

datos de paro probablemente mejorarán pero por qué mejoran porque baja

y no hay sustitutos demandando esos empleos es uno de los factores hay muchos más se están haciendo las cosas

pero no olvidemos la importancia de la demografía en todos los campos y sobre todo en este del año pasado a este ha bajado la demografía los nacimientos por ciento y nosotros estamos haciendo infraestructuras y yo no he visto en ningún informe sobre todo de

y laboral también laboral que esté teniendo esa perspectiva vamos a tener que inventar formas nuevas de hacerlo y las formas nuevas para mí para nuestro grupo no son por ejemplo

en juntar colegios y hacer que los niños tuvieran que andar en autobús todos los días veinte

tenemos un ejemplo muy bueno de una situación de este tipo en la comunidad que tiene los mejores resultados de toda españa que es castilla y león

ese problema que nosotros vamos a tener enseguida que es el de la dispersión geográfica y la poca población y lo han resuelto con lo que se llama eskola txikiak es decir los antiguos colegios que

clases y de esa forma podían tener un número suficiente eso que parece cosa del pasado es lo que se está implementando en castilla y león para luchar contra este problema y están teniendo los mejores resultados de españa pero todo esto hay que empezarlo a discurrir ya lo que no sé si se han dado cuenta ha pasado un año y estos cuatro van a pasar volando

por favor empecemos a trabajar ya vamos a votar a favor de la enmienda consensuada muchas gracias eskerrik asko bengoechea

presentada por bildu sobre la necesidad de materializar la propuesta realizada por el departamento de educación en la mesa sectorial de educación y de impulsar el diálogo hombre la presentación de la misma indica que lo que es evidente es que hay es voluntad de iniciar y poner en marcha esa negociación

positivo sobre este tema tuvimos la ocasión

y participación con el objetivo de alcanzar un pacto por la educación y también de escuchar la comparecencia de la viceconsejera de administración y servicios en la que nos expuso la propuesta realizada por el departamento en la mesa sectorial y nos explicó la visión que el propio departamento de educación

como ustedes sabrán el veintisiete de septiembre el departamento de educación y los sindicatos se reunieron en la mesa sectorial de funcionarios docentes tal y como se había acordado desde el verano el departamento convocó la mesa con el fin de trasladar su propuesta de los compromisos adquiridos y ahí se pusieron encima de la mesa unos cuantos compromisos que no me parecen precisamente menores usted los ha dejado pasar como si no tuvieran mayor importancia pero creo que son sustanciales y paso a leerlos cinco mil plazas docentes a ofertar a través de distintas ope en la presente legislatura lo que supone un incremento de las plazas ofertadas

unas que por cierto ustedes quisieron paralizar en su momento una apuesta por la estabilidad educativa reduciendo la interinidad en diez puntos y pasando de un veintisiete por ciento de tasa de interinidad a un diecisiete por ciento en la presente legislatura por otro lado que haya sustituciones de los docentes desde el primer día tanto en educación infantil como en educación primaria

y parece que esto es el caos absoluto y la nada más tremenda y es evidente que son temas que tienen sustancia y entidad y que los propios agentes valoraron positivamente

manteniendo la plaza del personal hasta que se cubra por oferta pública de empleo y a nosotros nos parece que esas propuestas de avance y mejora son compromisos firmes del departamento que esperamos que sean llevados a cabo y que esperamos por supuesto que se cumplan

y prueba de ello son las huelgas convocadas hasta ahora y la de carácter general que sigue convocada

y es cierto que la huelga es un derecho democrático y que cuando alguien se manifiesta es porque no está de acuerdo con las medidas que se están llevando a cabo lo que quiere decir que siempre hay un trasfondo que justifica esas iniciativas y es lo que está ocurriendo en esta ocasión los sindicatos tienen como reivindicación fundamental el incremento de plantilla

la tienen los trabajadores de la red pública por lo tanto lo que hay que tratar de hacer es buscar un equilibrio entre el legítimo derecho a la huelga y dejar que la parte social aporte sus propuestas y también evitar dar una imagen negativa y de conflicto permanente de la enseñanza pública vasca

pueden tener y los tienen en muchas ocasiones objetivos inmediatos diferentes pero siempre entiendo yo que comparten un objetivo superior que es alcanzar la excelencia educativa en nuestro país y la excelencia formativa de alumnos y alumnas y por lo tanto se deben alcanzar acuerdos y soluciones viables

buena disposición por ambas partes por la administración y por la parte sindical porque la problemática que se generan entre los docentes públicos y sindicatos

o sus derechos laborales siempre puede ser un punto de inflexión en una negociación pero a mí me preocupa la sensación de inestabilidad

y cuando una red en este caso la pública genera con carácter casi permanente

inestabilidad quien se beneficia inmediatamente son las otras redes educativas de este país porque un padre o una madre cuando va a matricular a su hijo o a su hija en un centro educativo elige la oferta educativa por muchos factores

pero también por la estabilidad que este centro ofrece y cuando la red pública

cuando la red pública está en continuas convocatorias de huelga permanentes proyecta una imagen de inestabilidad y de inquietud que puede afectar y de hecho lo hace negativamente a las matrículas en la red pública por ello creo que había que tratar de evitar la conflictividad

a la red pública con esto no quiero echar las culpas solamente sobre la parte sindical aquí tiene responsabilidad la parte sindical y por supuesto la administración educativa también

colectivo de los padres y madres vascos es que la red concertada es una red más segura más tranquila no tiene conflictos y le ofrecen mayores garantías yo creo que eso no es así pero no quiero

y por lo tanto como se ha iniciado ya esa andadura de la mesa sectorial lo bueno es dejarla andar es un avance que se disponga de esas herramientas para llegar a acuerdos se reúne y se negocia sobre aspectos de relevancia para el sistema educativo para una mayor calidad de nuestra enseñanza tanto para el alumnado como para los docentes en la que la comunidad educativa puede aportar y de hecho lo está haciendo sus ideas y su conocimiento una mesa plural en la que se debata y se habla con el fin de alcanzar

buscando las mejores soluciones y en el bien entendido de que tanto una parte como la otra

de la escuela pública vasca y este debe ser un proceso que incluya a todos los agentes afectados

pero como he dicho hay que dejarle andar se acaba de formar y hay que darle un margen de tiempo y de mejora y por de pronto valorar la experiencia positivamente

distintas voces y distintas opiniones para llegar a acuerdos ese debiera ser el principio de lo que todos esperamos que suceda a medio plazo que es ese pacto educativo

ya sabemos que no va a ser desde luego ni fácil ni sencillo conseguirlo

esto que se apuesto en marcha es una medida que valoramos positivamente y que nos parece un procedimiento adecuado para comenzar porque estamos en los comienzos ya sabemos que existen dificultades y mucha desconfianza por parte de los sectores que están representados en esos grupos de trabajo

por ser cuerpo docente como sindicatos como administración como red pública como concertada etcétera etcétera porque todos los sectores

y confiamos en que cada grupo de trabajo sepa cuál es el fin común y trabaje para ello

para poder ser eficaz ser eficiente y ser atractiva para el alumnado vasco para que pueda ofrecer una educación de calidad y no estar sujeto a los vaivenes políticos de cada momento porque sino acabaríamos con la educación pública vasca hay que dotarla de garantías para garantizar un horizonte porque eso

que atañe a toda la comunidad educativa eso es lo que hemos querido reflejar en la enmienda

finalmente con el partido popular una muestra de confianza en ese trabajo de la mesa sectorial un compromiso de hacer efectivo los compromisos que ahí se adquieran y

que es conocer mediante ese estudio cuál va a ser el impacto demográfico que se va a producir en euskadi

en la planificación educativa muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

administrazio eta zerbitzuetako langileak bostehun eta hirurogeita zortzi pertsona y cada uno de esos colectivos se rige por un sub convenio o acuerdo regulador de condiciones laborales a la par que sus foros de negociación se remiten a sus respectivas mesas sectoriales o mesas de negociación en la que obviamente la representación sindical varía y la disposición a la negociación por parte del departamento

y en el último año ha convocado diversas reuniones con los representantes sindicales de cada uno de los colectivos mencionados

zioen ubera andreak en esta legislatura se han convocado a los sindicatos a las siguientes reuniones funcionarios docentes dos comisiones de planificación y tres mesas sectoriales laborales docentes y educativos dos mesas paritarias laborales docentes de religión una mesa negociadora laborales de limpieza y cocina

pero como el tiempo es limitado voy a centrarme principalmente en el colectivo de funcionarios docentes por ser el que engloba a la mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras remontémonos a la décimo legislatura dos mil trece dos mil diecisiete a la situación económica de entonces

desde principios de la pasada legislatura el gobierno vasco comenzó la tarea de negociación de un nuevo acuerdo que renovara el suscrito en dos mil diez y para ello se hicieron varias reuniones de la mesa sectorial

objeto de nueva negociación debido a la situación económica que nos tocó vivir como sociedad así como la imposición de la normativa básica

como pudiera ser la formación del profesorado la euskaldunización del sistema la mejora de licencias y permisos se frustró a partir de ese momento los sindicatos respondieron con su inasistencia no obstante como firme defensor de la negociación y el trabajo conjunto para avanzar en la calidad del sistema en la once legislatura el departamento volvió a convocar las diferentes mesas

el máximo posible entonces teniendo en cuenta la tasa de reposición y se derivó la oferta a un único cuerpo docente el de maestros y maestras y el gobierno vasco lo hizo

y a pesar de hacer una sólida apuesta por las convocatorias públicas de empleo como instrumento para la estabilidad del personal así como de los claustros escolares

centrales sindicales mayoritarias decidieron realizar sendas convocatorias de huelga y la primera de ellas fue en marzo de este año la siguiente mesa sectorial se desarrolló el cuatro de mayo

uno de esos temas fue el análisis de la interinidad a fin de buscar fórmulas para el aumento de la estabilidad de las mismas dicho análisis arroja que la interinidad roza el veintisiete por ciento entre los funcionarios docentes que sin duda debemos ir reduciendo progresivamente

en la presente legislatura el máximo posible en aquellas fechas también se trasladó una propuesta de trabajo en torno a la planificación de las rpt

de la formación profesional es decir se trasladaron propuestas concretas actuaciones plausibles a la vez de que gran relevancia para los centros educativos y para nuestro profesorado

pero la respuesta que ha recibido el gobierno ha sido la convocatoria de diversas movilizaciones

hablo de aquel famoso otoño caliente que nos anunciaron en primavera y digo esto porque lo cierto es que la mesa sectorial coincidente

se emplazaron para una próxima reunión al inicio de este curso escolar sin que se haya esperado a su celebración esta afirmación la realizo

de atender a un interés mayor como es la normalidad en la atención a nuestro alumnado esto es a un interés mayor

no obstante en el contexto actual se celebró la reunión de la mesa sectorial de veintisiete de diciembre en la que se presentó una propuesta más desarrollada una propuesta integral

se trata de una propuesta viable y jurídicamente defendible es fundamental huir de abstracciones y de hipótesis y centrarnos y adquirir compromisos que realmente puedan cumplirse a la hora de elaborar y hacer esta propuesta el departamento ha partido de un principio un compromiso y una convicción el principio de realidad el compromiso de velar y garantizar una mejor educación y la convicción es que nuestro profesorado

por eso han de ser los mejores cualificados y deben de gozar de buenas condiciones laborales y el gobierno es el primer interesado en ello en qué consiste esta propuesta

tras analizar la posibilidad de incrementar las plazas inicialmente planificadas

conforme a la tasa de reposición del cien por ciento y tras la posibilidad que se ha abierto en el ámbito de servicios prioritarios de una tasa adicional

a futuras ope a lo largo de esta legislatura cinco mil todas las posibles en estos momentos

así mediante la aplicación y ejecución de esta tasa adicional se producirá una reducción en la interinidad en diez puntos pasando de un en torno del veintisiete por ciento a un diecisiete por ciento otra propuesta para favorecer la estabilidad es el nombramiento de interinos hasta cobertura el departamento solicitó a los sindicatos su opinión sobre la propuesta que por parte del departamento se trasladó en la mesa sectorial de junio y que se resumía en el compromiso de generalizar la del nombramiento de interinos

otro aspecto de gran relevancia al que se ha comprometido el gobierno vasco es la modificación del régimen de sustituciones en la que también ahora además de

y cuál ha sido la oferta planteada por los sindicatos en el curso dos mil dieciséis dos mil diecisiete la propuesta de los sindicatos ha sido huelga el veintidós de marzo huelga el dieciséis de mayo huelga veintitrés de mayo en el curso

la propuesta ha sido huelga el nueve de noviembre en haurreskola huelga el dieciséis de noviembre el personal de limpieza y cocina

en todos los colectivos la que veremos en próximas semanas y como no huelga hoy treinta de noviembre lastima da energia hori guztia negoziazio mahaira ez bideratzea askoz ere eragingarriagoa izango bailitzateke respecto a otras cuestiones que se mencionan

con este debate se habla de los ratios que se aplican

como he dicho más de una vez que los ratios que se aplican son los recogidos en el acuerdo regulador de las condiciones laborales

el gobierno vasco ha defendido y mantenido nuestra propia política de ratios mucho más ventajosa y adecuada que la establecida en el estado respecto a la inversión la educación junto con la salud y las políticas sociales son una prioridad del gobierno así lo debatíamos hace quince días y además quisiera recordar que el presupuesto en materia de educación no ha dejado de crecer en los últimos años en euskadi se invierten nueve mil ochocientos sesenta y ocho euros por alumno mientras la media europea es de nueve mil trescientos cincuenta y tres euros por alumno

y aún así y lo dije en aquel debate en nuestro caso ya no se trata de una mayor inversión que también sino de una inversión adecuada y efectiva de una utilización más eficiente de nuestro personal y de nuestros recursos

y mientras debatimos el profesorado hoy y otros colectivos en otros momentos y también para el día doce hay huelga desde aquí desde elkarrekin podemos también todo nuestro apoyo una huelga sí por condiciones laborales claro que sí faltaría menos por mucho que desde el gobierno

mensajes nada inocentes tampoco sobre las condiciones laborales de los profesores y de las profesoras pero también

educativas para la educación pública de carácter digno porque el problema de fondo que subyace es que hasta hace muy pocas semanas

a la mesa en los últimos meses y que el problema ahora es que las propuestas que se hacían eran y son del todo

y trabajadores y trabajadoras del sector público y aquí en este punto para dejar las cosas claras sí que me gustaría

a las mesas y que donde se tiene que negociar es en esas mesas de negociación entre el gobierno y la parte social pero tampoco eso nos impide al parlamento acompañar las reivindicaciones

en otros debates y apoyar las demandas que en definitiva son las demandas que vienen se analizan que son las que se necesita por parte de la educación pública para avanzar en su calidad porque

lo decía y es que cuando las movilizaciones no cesan algo está pasando y

sobre ese tema y las percepciones evidentemente percepciones son y son discutibles y son debatibles pero yo creo y creemos que

de mejora y lo hemos dicho en la comisión de educación en este propio pleno y unos sitios donde mayor se refleja son en los presupuestos tanto en el cuánto como en el dónde se invierte

un sistema educativo que tiene dos realidades muy claras unos presupuestos que al menos en materia

la historia y son unos presupuestos que evidentemente no están resolviendo la conflictividad que hay además reivindicando la parte más bonita de esa palabra de conflictividad que es un conflicto democrático de una parte social

o ineficientes por parte de un gobierno que son las movilizaciones y las huelgas del personal docente y educativo que está asqueado de la política

hay un debate que aunque sea el treinta y cinco aunque sea el veintisiete en todo caso

esa parte social con la no cobertura de las bajas del primer día es verdad que la parte ahora hay un compromiso que la parte de educación infantil y primaria se va en la parte de la educación primaria

pendiente que está molesto esa parte sindical también con que los recortes

viendo revertidos porque también desde un punto de vista cualitativo y no solo cuantitativo el panorama

es desolador porque yo creo que ni siquiera con la estética se está teniendo cuidado que también hay que tenerla en cuenta

que mientras la educación pública se mantiene en una situación muy parecida se está aumentando en un dos por ciento el presupuesto para los conciertos educativos

en global los conciertos educativos encima bajan pero el presupuesto sube

realidades y que el fortalecimiento de la escuela pública aparte de con declaraciones aparte de con decretos también se tiene que hacer con presupuesto que el fortalecimiento de la escuela pública se tiene que hacer

pública no creemos en este punto que aumentar la financiación de los conciertos educativos sea el camino para fortalecer

pública más cuando eso va evidentemente en detrimento de la educación pública porque pregunten si no en miribilla pregunten en gasteiz pregunten en la parte vieja de donostia lo que opinan sobre esto

en educación sobre el total de la riqueza de euskadi del país ha decrecido de manera alarmante

ya no es que nos tengamos que acercar al seis por ciento es que estamos muy lejos todavía de ese seis por ciento que recomienda la unesco

una propuesta no de ley para debatir el incremento del cero coma cinco por ciento del presupuesto en materia

aquel debate tanto aquel debate como en los presupuestos lo que indican es que no hay voluntad que tenemos dos realidades totalmente diferentes o dos opiniones totalmente diferentes

podemos y que no hay avances por lo menos en esa materia por tanto vamos a apoyar la iniciativa de euskal herria bildu como digo desde el respeto al escenario de negociación que se tiene que hacer en las mesas entre los sindicatos y el gobierno

de todas maneras esa proposición que viene a acompañar ese proceso y que viene a que ese proceso se materialice luego en los presupuestos de este año

pues señora ubera tiene usted razón en una cosa que además lo he reconocido varias veces que yo
en una situación hasta cierto punto incomoda porque parece que estoy defendiendo un proyecto

estoy de acuerdo con usted en lo que ha dicho que la educación

la educación es la mejor herencia que dejamos a los hijos pero usted me dice que vale que hoy toca hablar de la educación pública vasca

que hasta que yo no he mencionado en mi primera intervención que existe otra red aquí nadie había adjetivado educación pública se hablaba

la escuela vasca la escuela vasca la escuela vasca como si no hubiera más y por eso yo me he visto obligada que sí que había más pero vamos desde luego yo creo que también

y que muchos de los planteamientos de los sindicatos

pero que debiera ser también para secundaria la temporalidad en eso podemos estar de acuerdo pero hay cosas que veo bueno los esfuerzos que está haciendo el departamento pero lo que yo no quiero tampoco

el hecho de que no se llegue a un acuerdo sea una excusa para no tomar ninguna decisión hay que tomar decisiones

como los sindicatos no quieren como no se me sientan como no sé me qué todo paralizado no hay que tomar decisiones luego hay otra cosa que tampoco me agrada y que yo creo que todos hacemos algo

es vasar el debate en juicios de intenciones yo creo que ellos lo hacen porque yo creo que como en madrid

por favor a mí me parece que degrada la política el hacerla

y también creo no tanto por la intervención de euskal herria bildu como por la intervención de elkarrekin podemos que lo que se pretende

con este tipo de discursos es penalizar de elección en estos momentos la comunidad autónoma del país vasco euskadi invierte por alumno

en la escuela pública más de lo que se invierte en toda españa creo que estamos un treinta por ciento arriba

donde en un sitio se invierte setenta o la media es setenta

es decir teóricamente la escuela pública está bien dotada de fondos ahora veamos cómo los utilizamos esa es la clave cómo los utilizamos pero cuando le oigo al señor de podemos decir que la escuela pública está mal porque existe la concertada pues la verdad eso me parece que no es de recibo

entonces me ratifico lo que nosotros pedimos es que se negocie que se atiendan a las

que son razonables y justas que no se tome como excusa la falta de acuerdo para no tomar decisiones cuarto

se tenga una mirada amplia sobre todo lo que es la escuela vasca que es mucho más que su mitad es también su mitad

y por último que cuando tomamos estemos tomando decisiones y haciendo planes entendamos que serán muy coyunturales y muy pasajeros

por lo menos durante los próximos diez años es lo mínimo muchas gracias

bueno señora ubera yo no he querido aquí criminalizar a los sindicatos por convocar huelgas iría en contra de mis propias convicciones

hacer una reflexión sobre si la conflictividad permanente en la escuela pública no acaba dañando la imagen de la propia escuela pública a la que todos décimos defender

a sus hijos no optan por la escuela concertada porque les da más tranquilidad y más estabilidad y creo que eso es algo que tiene que tener en cuenta la administración y los sindicatos

que hace esa reflexión antes de decidir a qué centro escolar manda a los hijos

qué pasa en todos los sitios en los tres territorios sean zonas rurales o sean zonas de otro tipo y por lo tanto creo que eso es un elemento de reflexión y después yo creo que en estos temas a la hora de ver la realidad esto es como lo de los borrachos y la botella

y en dibujar una visión catastrofista de la situación

catastrófica no puedo coincidir con usted y vuelvo al tema de la negociación colectiva y de la imagen creo que es una mala sensación la que se genera

la mesa de negociación de los centros concertados ayer mismo

y respetando y defendiendo el derecho que todos tienen a defender sus intereses creo que por encima del interés individual que es perfectamente legítimo tendríamos todos que pensar
en el interés de lo que más nos importa que es el futuro de la educación en este país eskerrik asko pastor jauna

nos ha dicho que el gobierno vasco no se ha sentado hasta las últimas semanas a negociar nada yo creo que usted no ha estado muy atento cuando yo hablaba en mi primera intervención voy a obviar lo de la décimo legislatura voy a centrarme en la legislatura

funcionarios docentes dos comisiones de planificación catorce de febrero y quince de marzo

laborales docentes educativos dos mesas paritarias veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis y veintisiete de febrero del dos mil diecisiete

laborales limpieza y cocina dos mesas paritarias veinticuatro de noviembre y treinta de marzo varias mesas de trabajo territoriales

o esto viene de muchos meses y años atrás las distintas mesas se han reunido con normalidad con las tensiones y discrepancias normales en una mesa

sindical el déficit de normalidad en estas reuniones ha podido venir marcado por las ausencias puntuales

saiatuko naiz horietako batzuei puntuz puntu erantzuten interinidad hay quien dice que la interinidad es aproximadamente del cuarenta por ciento

porque los datos aportados por algunos sindicatos no resisten un mínimo análisis racional y objetivo ya que incluye plazas de jornada parcial y de sustituciones que necesariamente han de ser cubiertas por personal interino por ejemplo

tal y como está establecido en el acuerdo docente tiene que estar necesariamente

lo mismo podría decir de los liberados sindicales que tenemos en nuestro sistema que esas plazas están ocupadas por personal interino lógicamente

el gobierno vasco siempre ha propuesto las plazas permitidas por la normativa en cada momento ante la necesidad de otorgar una garantía jurídica a los candidatos y candidatas que se presentan estamos hablando de una posibilidad

son ustedes los que dicen apostar por el todo público los defensores del público cien por ciento los que están

personas en esta legislatura respecto a los ratios vuelvo a decir que son los ratios

y es muy sencillo por ejemplo tenemos un aula con diez estudiantes y un docente si se produce un aumento de siete estudiantes seguiremos teniendo un aula y un docente

y esto es lo que está sucediendo ha aumentado el número de alumnos y aumentado también

lógicamente respecto a las propuestas entendemos que estamos ante una propuesta viable y jurídicamente defendible

que están ustedes tratando de trasladar las reclamaciones sindicales y laborales a las familias al alumnado están confundiendo deliberadamente reclamaciones laborales con reclamaciones del sistema y entendemos que no es ético ni sincero no entendemos que haya razones de índole laboral

eskerrik asko señora del pp la cuestión demográfica evidentemente que es una cuestión que nos preocupa a todas pero toda la política pública hay que hacerlo basada

sensación compartida o una idea compartida por todos los grupos que también aspiramos a revertir esa tendencia demográfica que tiene euskadi yo creo que ahí coincidimos y creo que

han pactado los tres partidos que se sitúan a mi derecha una serie de desgravaciones

para el tema de las ayudas

donde para revertir ese tema demográfico dónde están las políticas de empleo de calidad dónde están las políticas de educación pública que ayuden también a la conciliación familiar dónde están las políticas de mejora de las haurreskolas dónde está todo eso pues entonces

será interesante leerlo yo creo que no vamos a revertir esos o sea que bueno yo digo por rebajar un poco las expectativas de lo que han pactado

se puede estar hablando pero yo creo que sinceramente señor pastor creo que coincidimos más que

ha dicho pero es que la mala imagen lo que está realizando la mala imagen es desde una defensa radical que yo creo que hacemos

de la educación pública y de la calidad que también tiene evidentemente la mala imagen es no hacer el margen de mejora que tienen es no aplicar el plan de obra como se tiene que aplicar es tener las condiciones laborales que no estamos hablando salariales sino condiciones laborales

del personal y lo de la conflictividad pues bueno usted y yo usted quizás sepa más que yo de la dialéctica pero sin movilización

no hay negociación con el gobierno y no se arranca absolutamente nada por lo menos a un gobierno como el que tenemos en los últimos años

la última rueda de prensa que dieron al menos cuatro de los sindicatos que están convocando de doce reivindicaciones que hacían en esa rueda de prensa una salarial que es a lo que suele ir cuando hablamos de temas

temas que afectan a la calidad educativa como el tema

el tema de los ratios el tema de la financiación el tema de heziberri etcétera o sea solo había una reivindicación que podríamos llamar salarial señora berriozabal evidentemente que nada es casualidad o sea cada grupo tiene

nosotros apoyamos esa reivindicación y sin ningún tipo de vergüenza y vamos y de cara

que ustedes se refieren evidentemente hay un principio de realidad que tiene el gobierno ya lo decía el otro día en la comisión hay otro principio de realidad que tiene al menos toda la parte sindical

de trabajadores y trabajadoras ciudadanos y ciudadanas vascas un principio de realidad que tiene también en la comunidad educativa representada por ejemplo por la asociación de madres y padres de la escuela pública y otro que tiene el gobierno o sea no hay solo un principio de realidad nosotros pues sí pues mira coincidimos

la representación de los padres y madres de la escuela pública y en cuanto a que si viene tarde o no viene tarde también se refería a la iniciativa que presentaba nuestro grupo la semana pasada

ahora se ha acabado el plazo de enmiendas el presupuesto no estaba aprobado yo creo que es un momento adecuado para que se debatiera bueno si tenían el acuerdo pactado

que no han contado pues igual tienen la oportunidad de contarlo ahora pero es que las iniciativas vienen al pelo

en esta cámara sin más repito que apoyaremos la proposición apoyamos
cómo no las reivindicaciones que tienen los sindicatos y no venimos aquí a defender a los sindicatos y a la parte social porque ya se defiende sola y se está defendiendo ahora mismo en la calle eskerrik asko eskerrik asko

sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos espacios públicos edificaciones y sistemas de información y comunicación

por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en el transporte contribuyó a avanzar en la consecución de productos bienes entornos

la convención de las naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de plena aplicación y vigencia como parte de nuestro ordenamiento jurídico desde su ratificación

en el ámbito de los derechos humanos y como condición para que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida sin embargo después de veinte años son todavía muchas las personas en euskadi que no ven garantizado su derecho a participar plenamente y en condiciones de igualdad en la vía política económica social educativa

por la ausencia de condiciones de accesibilidad universal en los productos bienes entornos y servicios generándose situaciones de exclusión y desigualdad social

jartzea barne dela cuatro el parlamento vasco

de la accesibilidad universal y en particular al gobierno vasco para liderar e impulsar esta iniciativa estrategia que partiendo de un diagnóstico de situación

en especial con las entidades que representan a las personas con discapacidad los objetivos y medidas necesarias

universal el parlamento vasco insta a las instituciones públicas a garantizar el pleno y efectivo cumplimiento de la ley veinte barra mil novecientos noventa y siete

así como a realizar una evaluación y actualización en los aspectos que permitan avanzar en la garantía estricta del principio de accesibilidad universal

impulsando asimismo políticas de investigación y evaluación que contribuyan a disponer de indicadores e información real y actualizada

de las políticas y medidas de promoción de la accesibilidad universal siete el parlamento vasco insta a las instituciones públicas y privadas

tercer sector social que representa a las personas con discapacidad en el diseño ejecución seguimiento y evaluación

han evolucionado como en ninguna otra enfermedad el miedo el estigma y la discriminación

que viven en euskadi y a las nuevas infecciones que en estos momentos se están produciendo en nuestra sociedad

al mismo ritmo el parlamento vasco renueva su compromiso frente a la epidemia del

y en concreto a la eliminación de todas aquellas barreras que pueden promover el estigma la discriminación

del ejercicio de los derechos fundamentales que la constitución establece las personas con

vih sida se enfrentan a numerosos problemas sociales y jurídicos derivados de la confusa calificación de la infección

esta calificación desfasada repercute en todas las esferas de la vida de las personas

funcionando como barrera para el acceso al ejercicio de derechos y libertades

ámbitos como el acceso a la función pública en especial a la ertzaina los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y de las fuerzas armadas las limitaciones en el derecho al trabajo en especial en las profesiones sanitarias que realizan procedimientos invasivos las exclusiones en la contratación de seguros de salud o de vida

ofertados al público en general las intromisiones en su intimidad personal y en sus datos de carácter personal la dificultad para ejercer el derecho a adoptar a acoger